la situación que acabo de describir siendo lo positiva que es dista de ser

como propongo explicarles seguidamente en efecto recordarles a ustedes que el artículo

de dirigir recomendaciones o recordar los deberes legales a los órganos competentes a los funcionarios o a sus superiores para procurar corregir datos ilegales o injustos o lograr una mejora de los servicios de la administración por ello si al examinar quejas llegamos a la conclusión de que la actuación administrativa no ha sido correcta

desafortunadamente el cumplimiento de la recomendaciones y sugerencias emitidas

dos mil dieciocho tan satisfactorio como hubiéramos deseado

solo veintiséis fueron aceptadas sesenta no lo fueron y treinta y seis estaban pendientes de respuesta de decisión definitiva a la fecha de la presentación del informe

en los últimos años las recomendaciones emitidas en el área de inclusión social este año dos mil dieciocho alcanzaron un porcentaje que supera el cuarenta y cuatro por ciento del total de las emitidas debido como siempre al elevado número de expedientes tramitados

muchas de estas recomendaciones no aceptadas versan sobre un mismo tema

quiero destacar también la importancia que esta institución otorga a la necesidad de motivar adecuadamente las resoluciones que dirige a las administraciones públicas en particular cuando

el ararteko siempre ha mantenido que la carencia de capacidad coercitiva conlleva la necesidad de desarrollar mayores esfuerzos dialécticos

de contrarrestar las discrepancias jurídicas y de reiterar nuestros argumentos cuando observamos reticencias a la hora de cumplir recomendaciones y recordatorios del ararteko estas son las reglas del juego aceptadas por todos sin embargo una cuestión es que la administración no comparta la interpretación jurídica

y que argumente cuáles son sus motivos de discrepancia y otra diferente es que la administración

en el año dos mil dieciocho veintiuno recomendaciones se dieron por no aceptadas debido a la falta de contestación casi un veinte por ciento de las recomendaciones de las que se ha hecho el seguimiento

al comunicar al ararteko su nueva citación no realiza ninguna valoración

aunque el número no es llamativo como digo no puedo ocultarles que me preocupa esa realidad

afectan al ejercicio de las funciones que han sido encomendadas al ararteko

asimismo estas conductas muestran una actitud desconsiderada para con aquellos ciudadanos y ciudadanas que utilizando uno de los mecanismos de los que se ha dotado en euskadi el estado de derecho al resolver los problemas han acudido a nuestra institución solicitando el amparo para que se le reconozcan sus derechos y se cumpla el ordenamiento jurídico bien dicho esto como ya he adelantado en euskera

siquiera severamente a algunas de las cuestiones más significativas que han afectado

problemas que afectan a niños niñas y adolescentes a la igualdad e integridad de las mujeres por la inclusión social de las personas desfavorecidas a las reflexiones

energética y mencionaré por último las iniciativas desplegadas por

el número de experiencias de quejas en los que de manera expresa se cita la presencia o se encuentran implicados niños niñas y adolescentes alcanzó en dos mil dieciocho la cifra de setecientos veintinueve

que supone un veintiocho por ciento de todos los expedientes algo más del cuarenta y uno por ciento tiene que ver

que permiten a los niños y niñas un nivel de vida adecuado concretamente con cuestiones vinculadas al sistema de garantía de ingresos y de vivienda

otro treinta y ocho por ciento se refiere a problemas en el sistema educativo y el veintiuno por ciento restante se

entre los servicios sociales políticas de apoyo a las familias sistema de salud

una realidad compleja que interpela a toda la sociedad que tuvo lugar el año pasado en el marco de los cursos de verano de la universidad del país vasco

como quedó acreditado por el récord de personas asistentes según los datos de los que disponemos fue el curso

y dejó como resultado unas conclusiones en clave de línea de trabajo futuras y el compromiso del ararteko de seguir impulsando mejoras

muestra evidente de este compromiso es el proyecto abordado por la institución de la que me honra ser titular de elaborar a lo largo de dos mil diecinueve

de actuación interdisciplinar e interinstitucional

y cuya propuesta técnica es ya objeto de un consenso muy avanzado ya que constituye una demanda reiterada de los agentes claves que intervienen en euskadi como resulta patente cada día

hay que reconocer que se han producido en euskadi avances innegables en los últimos años pero persisten estructuras desiguales de poder

es todavía insuficiente y la precariedad laboral de las mujeres y la feminización de la pobreza siguen siendo realidades en nuestra sociedad

a los que la agenda política vasca debería a nuestro juicio atender prioritariamente la violencia contra las mujeres y el desafío de conseguir la igualdad económica entre hombres y mujeres es urgente desarrollar

según los datos que provienen de emakunde en dos mil dieciocho se contabilizaron en euskadi

por ser precisos mujeres víctimas de violencia es decir una media de una denuncia al día

la tenencia en el presente año no inspira precisamente

en euskadi el pasado año nos quedó el doloroso balance de dos mujeres asesinadas

fue asesinada en vitoria gasteiz por su expareja esta mujer tenía una hija y un hijo menores de edad

fue también asesinada ese día posteriormente el día veinticinco de septiembre maguette veinticinco años fue asesinada en bilbao por su marido

hoy aquí quiero dedicar este tiempo del que dispongo para dedicar un pequeño recuerdo a estas víctimas conocidas

destacando eso sí la firmeza que la sociedad vasca demuestra cada día contra la violencia machista y contra las agresiones sexuales

no ha obtenido el desarrollo esperado en dos mil dieciocho quedando aún sin poner en marcha muchas medidas y las previstas euskadi a nuestro juicio

que pueda mejorar la eficacia de la lucha contra esta lacra social sin perjuicio del avance de las reformas

en el ámbito estatal en ese contexto se hace especialmente necesaria la anunciada renovación del compromiso de todas las instituciones firmantes del acuerdo interinstitucional actualmente vigente en euskadi esto servirá para adaptarlo al nuevo marco

estatal así como a los requerimientos internacionales y europeos y dotándonos de unas bases sólidas y en favor dispensable coordinación institucional

igualmente urge avanzar en las reformas o iniciativas legislativas vascas orientadas a asegurar e intensificar la atención apoyo y protección de las víctimas

singularmente en materia de servicios sociales educación sanidad protección policial así como la coordinación de estos servicios con la justicia

y apoyar y proteger suficientemente a las mujeres

y emprender el complejo camino de la salida de la violencia en tal sentido resulta necesario a nuestro juicio agilizar el proceso de reforma de la ley cuatro barra dos mil cinco de dieciocho de febrero para la igualdad de hombres y mujeres a través

por emakunde la urgencia de esta reforma tiene su fundamento en la necesidad de adaptar nuestro sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia

muy especialmente a la conformación de un sistema vasco de acreditación de la condición de víctima que no obligue a las mujeres a pasar por la denuncia penal y les permita

acceder a prestaciones que son necesarias para obtener apoyo y lograr

también quisiera referirme al ineludible

contra la brecha económica y afrontar la cuestión de la falta de equidad en el reparto

el ararteko considera indispensable avanzar en las medidas previstas en la estrategia vasca contra la brecha salarial

las medidas de toda índole que fueran necesarias incluidas las reformas normativas y legales

para ello resulta imprescindible que las administraciones vascas ejerzan un liderazgo en el camino hacia la

también es preciso tener en cuenta el impacto negativo que en la situación laboral de las mujeres y en la falta de equidad el reparto del trabajo de cuidado como trabajo no remunerado entre hombres y mujeres conviene recordar que las expectativas sobre la igualdad de género establecidas por la organización de las naciones unidas en la agenda dos mil treinta en el objetivo cinco

sostenible se orientan a afrontar el hecho contrastado

no remunerado supera con creces el triple para las mujeres que para los hombres

deben incidir mediante medidas de educación formación y sensibilización social así como facilitando la conciliación laboral y familiar y valorizando

en beneficio de la comunidad en su conjunto paso seguidamente a referirme

en dos mil dieciocho ante este parlamento titulado la transición energética del país vaco hacia un modelo sostenible

esa transición energética se plantea en un momento en el que los compromisos y acuerdos internacionales como el acuerdo de parís

marcan una hoja de ruta dirigida a rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero establecer cuotas de ahorro y eficiencia energética e impulsar el consumo de energías

en este contexto global la comunidad autónoma del país vasco debe estar a la altura del reto de la descarbonización de la sociedad que demanda la comunidad internacional

señala que el actual modelo energético vasco aunque es eficiente

está aún basado mayoritariamente en el uso de energías fósiles otro elemento a destacar es que las emisiones de gases de efecto invernadero si bien han tenido una tendencia a la baja en los últimos años han conocido un repunto desde dos mil diecisiete

y se sitúan en un seis coma dos por ciento por debajo de las emisiones del año mil novecientos noventa cabe señalar que el sector del transporte sigue siendo aquel en el que continúan creciendo las emisiones que se han duplicado

las derivadas del uso de vehículos en todo caso el consumo

continúa siendo bajo en comparación con la media del estado o de la unión europea en euskadi la cuota de renovables en el momento en el que se hizo el informe por lo menos

en el consumo final de energía se mantenía en el ocho por ciento del total

si se incluye en ese cómputo el tanto por ciento de energía eléctrica de origen renovable que euskadi importa de otros territorios

de las que me gustaría reiterar ante ustedes las siguientes

con los objetivos de la unión europea segundo euskadi debe avanzar por la senda del ahorro y la eficiencia energética tercero los poderes públicos vascos tienen que continuar y consolidar los esfuerzos ya iniciados en el ahorro y la eficiencia en sectores como el industrial

cuarto la transición en el modelo energético vasco requiere el impulso del consenso social que permite incrementar la producción de energía renovable en euskadi

entre instituciones agentes sociales y ciudadanía

la transición energética tiene que ser equitativa para todos los sectores y en especial para los colectivos más vulnerables finalmente la transición a una economía baja de carbono supone

para el desarrollo económico e industrial y la creación de empleo en la comunidad autónoma

con posterioridad a la finalización del informe quisiera

que se han producido en este ámbito por un lado la aprobación por este parlamento de la ley cuatro barra dos mil diecinueve de veintiuno de febrero de este mismo año de sostenibilidad energética por otro

acordada en sede parlamentaria el pasado catorce de marzo en la que se insta al gobierno vasco a que impulse los trabajos

por último el pasado treinta de julio de dos mil diecinueve el gobierno vasco ha suscrito una declaración institucional de emergencia climática y ambiental en la que plantea el objetivo de lograr que euskadi sea un territorio neutro en carbono no más tarde del año dos mil cincuenta

justa lo permita es preciso reconocer la importancia que estas leyes y declaraciones y es preciso que estos compromisos se plasmen en acciones locales urgentes e inmediatas para la reducción del uso de recursos fósiles

descarbonización de nuestra sociedad acciones que

que el país vasco ha mantenido una menor tasa de pobreza durante la crisis

prestaciones económicas de la renta de garantía de ingresos la complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social no obstante el crecimiento económico que se está se produciendo no es tal alcanzando todavía

personas en situación de exclusión social pertenecientes a minorías culturales familias monoparentales personas

personas con limitaciones funcionales discapacidad intelectual o problemas de salud física y mental

no debe excluir otro tipo de políticas que tengan como objetivo redistribuir la riqueza evitar la feminización de la pobreza y prevenir la exclusión social además estimamos necesaria la apuesta decidida por las cláusulas sociales

en especial de las personas con discapacidad el departamento de empleo y políticas sociales ha puesto en marcha medidas para facilitar la formación laboral así como la acreditación de la capacitación profesional destinada a colectivos vulnerables

es una directriz prioritaria para lograr la inclusión social de todas las personas se sigue detectando a lo largo del dos mil dieciocho un elevado número de personas no obstante

la recientemente publicada encuesta de necesidades sociales dos mil dieciocho también pone en manifiesto indicadores de pobreza que deben ser objeto de reflexión

para la garantía de ingresos y para la inclusión social en dos mil dieciocho no se logró avanzar

la modificación de esta normativa parece conveniente para adecuar las necesidades sociales incluyendo las mejoras técnico jurídicas

al afectar la población más vulnerable de nuestra sociedad y tener en cuenta además los compromisos y avances conceptuales y terminológicos incorporados a los diferentes planes del gobierno la normativa o anteproyectos ya aprobados y como decía antes el anteproyecto de reforma de la ley cuatro dos mil quince para la igualdad de hombres y mujeres

a cargo que denuncian no disponer de vivienda a eso se añade como he adelantado que los indicadores relativos al desempleo o a la renta media son también desfavorables

hacia las mujeres las políticas públicas dirigidas a la inclusión de las personas competen a diferentes niveles institucionales

en mejoras los servicios sociales municipales reciben demandas de ayuda

alojamiento recursos que son competencia de otras administraciones

múltiples dificultades e impacta en sus funciones de acompañamiento social

el mayor número de quejas que el ararteko transmita en este ámbito sigue afectando a la gestión de la rgi

en torno al diecisiete por ciento menos en la tramitación de algunos de los expedientes de queja se sigue constatando un control y vigilancia exhaustiva

y obligaciones que se deben cumplir para ser titular de las prestaciones rgi

las revisiones de los expedientes por parte de las oficinas de lanbide son según nuestra experiencia

sospechas sobre el cumplimiento de dicha responsabilidad pública

prestación económica en su integridad al cumplimiento de determinadas conductas y obligaciones

la propuesta de condicionar únicamente una parte de la prestación en situaciones de ausencia total de ingresos

que sufren los servicios sociales municipales y constituiría una medida valiosa en la lucha contra la pobreza infantil hay que mencionar que en una parte importante de las quejas cuya tramitación se terminó en dos mil dieciocho

había sido conforme al ordenamiento jurídico sin embargo siguen existiendo un número importante de intervenciones en las que se mantienen opiniones divergentes por lo que se han remitido recomendaciones y sugerencias

cuestión que me gustaría evocar en referencia a la dimensión europea

esta intervención en nombre del grupo popular agradeciéndole al ararteko

porque hay que decir que es un informe exhaustivo de fácil lectura y que además nos da una radiografía

de aquello que en lo que en euskadi o fallamos el gobierno o falla no lo acaba de hacer bien entonces es una radiografía que a la que pocas veces tenemos

tan detallada y tan completa mientras que solemos tener radiografías y no es un reproche de los logros del gobierno

a menudo pues ahora tenemos una radiografía del estado de la situación con lo que falla o

el ararteko ha explicado bastantes cosas de su informe pero claro en el tiempo que ha tenido no era posible hacer un recuento

qué es lo que nos satisface sobre todo del informe del ararteko para empezar queremos decir que las quejas han bajado drásticamente yo diría excepto en gipuzkoa que han tenido un pequeño repunte

en bizkaia han bajado de mil quinientos cuarenta y dos a unohirurehun eta hogeita hamairugarrena nos parece un logro

a quinientos noventa y dos nos parece también un logro parece que vamos mejorando en la relación entre las administraciones y los ciudadanos pero hay otro dato que quisiera señalar que

el ararteko hace recomendaciones lógicamente y las recomendaciones que las administraciones no aceptan no asumen

han subido entonces son el dieciséis coma setenta y cinco por ciento me dirán que no es mucho pero

como él decía hay un consenso sobre el puente que supone el ararteko entre los ciudadanos y la administración si leemos el informe con detenimiento veremos que cada una de sus resoluciones están muy articuladas entorno a todos los documentos jurídicos y muy bien

más del dieciséis por ciento de sus resoluciones se encuentren con el silencio o con

creo que eso es algo en lo que las administraciones vascas y especialmente el gobierno vasco que es al este parlamento controla debiera mejorar y hay otro dato que también nos estropea un poco la alegría de ver que han descendido las quejas y es el siguiente una persona se queja y lo primero que hace

es ver si esa queja está justificada o no bueno el año pasado el cincuenta y tres por ciento de las quejas se encontró que no tenían justificación es decir un

estar muy enfadado por algo pero el ararteko

eso fue el año anterior el cuarenta y ocho por ciento bueno

este año ha subido la cifra hasta el cincuenta y tres por ciento de las actuaciones que denuncian los ciudadanos que el ararteko encuentra incorrectas

es decir tenemos menos quejas pero de esas quejas tenemos un porcentaje bastante mayor en las que el ararteko

en la actuación quiero solamente en el tiempo que me resta que es muy poquito tocar dos temas

primero es el tema de las aes es decir hay que solucionar el hecho de la demora

viene ocasionado porque el gobierno no transfiere el suficiente dinero a los ayuntamientos para

entonces llega el mes de octubre y los ayuntamientos se quedan sin dinero y entonces tienen dos opciones

o esperar a que el gobierno envíe más dinero esta no es una forma correcta de actuar el ayuntamiento debiera disponer de dinero

y no en octubre que se produzca un cuello de botella otra cosa que nos ha parecido importante es el hecho de que teníamos la expectativa creada y se aprobó en este parlamento de la creación de dos nuevos juzgados de violencia

y no se ha materializado entonces los juzgados de violencia contra las mujeres están hasta cierto punto saturados y el último que creemos que es el departamento lo último que les voy a nombrar

más huecos más dificultades y que causa más quejas y que

ocasiona más frustración a los ciudadanos es el departamento de vivienda tenemos a sesenta y cinco mil personas inscritas esperando

en alquiler tenemos unos objetivos fijados para dos mil veinte respecto del número

que tendríamos construidos que por supuesto es que olvidémonos de ellos

es muy importante que definamos qué es una familia monoparental tenemos

sin definir jurídicamente y los ciudadanos lo necesitan en el campo de la renta de garantía de ingresos pero sobre todo y también en el de vivienda

insuficiencias en las respuestas de las administraciones

de todo el informe nos preocupan muchos aspectos pero nos preocupa especialmente porque lo consideramos estructural

estructural las carencias del departamento de vivienda muchas gracias eskerrik asko de bengoechea

gracias presidenta lehendakari sailburuok ararteko y personas que le acompañan señorías egun on guztioi

el trabajo realizado y la presentación del informe anual dos mil dieciocho en esta sede parlamentaria

recibir en este parlamento a su alto comisionado para la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de nuestras administraciones públicas

de esta institución que se configura como la intermediaria entre la administración y la ciudadanía

respuesta a las demandas quejas o consultas que la propia ciudadanía plantea en su relación con aquella con el objetivo

ante los poderes públicos así como realizar otra serie de actuaciones orientadas a la evaluación y diagnóstico de las políticas públicas en definitiva

que aporta un plus de control y de calidad democrática a nuestras instituciones públicas afortunadamente tenemos asumido que el sistema de derechos humanos

básico de nuestra democracia y de nuestra convivencia y es obligación de los poderes públicos trabajar en la optimización del propio sistema pero lo cierto

hace que las necesidades en ocasiones de la propia ciudadanía vayan por delante de las actuaciones de las propias administraciones y es aquí donde la labor proactiva y preventiva del ararteko promueve a que evolucionen y mejoren constantemente en el camino de prestar servicios de calidad y sobre todo de garantizar el ejercicio de los derechos y de combatir y eliminar las desigualdades la discriminación la precariedad y la exclusión social

informe se constata efectivamente que la actividad global desde el punto de vista cuantitativo ha seguido en el año dos mil dieciocho progresando como en los últimos años ya que las actuaciones

sigue en esa tendencia de incremento del ocho por ciento respecto al año anterior y esto no es más que la consecuencia de la confianza como decía creciente de la ciudadanía en la institución

señalar que además de que se han producido una ligera disminución en el ochenta y cuatro por ciento de los supuestos no ha sido necesaria la emisión

al haber sido resueltas en el curso de su tramitación lo que supone señorías que en nuestras administraciones acogen voluntariamente

planteado por el ararteko en este caso quiero destacar algunas cuestiones un par de ellas

mención al informe extraordinario sobre la transición energética del país vasco hacia un modelo sostenible lo hemos dicho siempre desde nuestro grupo y lo valoramos positivamente

hace necesario actuar en estos derechos llamados de cuarta generación que son prioritarios para el presente y el futuro de la sociedad y de la ciudadanía vasca en este sentido

y medioambiente se avanza en ese sentido y han sido remitidos sendos proyectos de ley de conservación del patrimonio natural y de administración

es necesario mencionar porque además también se hace en el informe y desde el ámbito de la justicia gratuita el ararteko avala el decreto ciento cincuenta y tres barra dos mil dieciocho de asistencia jurídica gratuita del departamento de trabajo y justicia que recoge

para la mejora del sistema esencial de justicia gratuita que garantiza la igualdad ante la ley el ejercicio del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva así como la integración social y destaco también de su informe quejas importantes en número

que provoca la actividad bancaria y aseguradoras que no son fiscalizables por la institución pero destacamos su implicación para asesorar a las personas

señalando también que desde el departamento de comercio y turismo se están dando también importantes avances en este sentido para proteger a las personas consumidoras y usuarias que quiero recordar somos todos

este camino es perseguir una promoción de un consumo responsable y la protección

compartimos absolutamente como no puede ser de otra manera la necesidad de reforzar la cultura de los derechos humanos

y remover todos los obstáculos para el ejercicio de los derechos de todas las personas con independencia de su origen raza orientación sexual identidad de género o diversidad funcional poniendo la mirada especialmente en ese fenómeno insoportable de la violencia machista que es como todos coincidimos la manifestación

y la protección de las mujeres y menores víctimas de violencia machista

decentes y democráticos y en ese sentido es imprescindible otorgar a las políticas de igualdad mayor fuerza vinculante más recursos más medios y mayor

que es necesario se apruebe en este parlamento a la mayor brevedad por último no puedo dejar de expresar

a todos los demócratas finalmente sacamos al dictador

debió estar así que reconocimiento justicia dignidad y memoria para todas las personas que lo dieron todo

repetir el agradecimiento al ararteko y a todo su equipo muchísimas gracias eskerrik asko gallástegui

como todo el trabajo que realiza la institución en su día a día en la defensa de derechos de la ciudadanía como decíamos en la comisión en la que ya abordamos este informe desde nuestro grupo ponemos algunas alarmas sobre lo que recoge y como tenemos poco tiempo voy a ser lo más concisa que pueda sabiendo que nos van a quedar

jarri behar zaio bere lanari más de nueve mil quejas presenciales casi cinco mil consultas telefónicas

al mismo tiempo más recomendaciones ignoradas por las instituciones un ocho por ciento menos de las recomendaciones atendidas que el año pasado y ojo son un cincuenta por ciento de las que se emiten

nos preocupan desde esta preocupación queremos señalar algunas cosas relativas a los diferentes apartados del informe en primer lugar

de dos mil diecisiete en las que se encuentran implicadas niñas niños o adolescentes de las que además casi la mitad tiene que ver

datos que deberían llamar la atención a este gobierno pero que no sabemos muy bien que se está haciendo porque año tras año hay cosas que siguen igual o peor

la mayoría de las quejas tienen que ver con la admisión del alumnado transporte y becas elementos fundamentales que reflejan las preocupaciones de la comunidad educativa del año dos mil dieciocho y que deberían orientar al gobierno a dar una respuesta clara

propuesta de las oficinas de información y matriculación única que propone el ararteko y que ha propuesto también nuestro grupo y han sido rechazadas por los grupos que sustentan al gobierno cuestiones respecto a hacienda por un lado y dado que la sociedad vasca ha tomado conciencia del grave problema que supone la corrupción del clientelismo también en euskadi como ya hemos dicho

y como tal debe de ser protegida y fomentada por los poderes públicos algo

hace imprescindible establecer mecanismos de protección a las personas que realizan dichas denuncias y que si bien se han establecido diferentes vías de recogida de información por ejemplo en lanbide

esto también lo dice el ararteko por otro lado y porque interpela de forma directa las competencias del gobierno es indispensable dice el ararteko ojo no yo realizar un mayor esfuerzo para tener en cuenta los distintos modelos de familia y tomar medidas fiscales y tributarias que reconozcan y protejan a familias como pueden las monoparentales

que es la necesidad de hacer la información accesible y las comunicaciones de las instituciones también accesibles algo que hemos abordado reiteradamente pero que continua pendiente

la necesaria transición energética en euskadi que presentó el pasado

también consideramos positiva la actuación en diversos temas ligados a la protección del medio ambiente cuya repercusión mediática y social es indudable nos referimos a la protección del lobo a las fumigaciones de los pinos y a la construcción

de actuar para favorecer unos intereses concretos en detenimiento del interés general y es importante que el ararteko les recuerdo que las leyes están para cumplirlas en materia de vivienda no me voy a extender porque ya

desgranando bien cómo se repite año a año la imposibilidad de hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda que la ciudadanía vasca tiene reconocida y aunque el señor arriola no está aquí esperemos que tome nota también preocupa que las viviendas públicas en régimen de alquiler se vuelvan un espacio de vulneración de derechos ante las posibilidades de desahucio de familias que no tienen como pagarlas conocíamos hace poco un caso en barakaldo de una mujer víctima de violencia machista y además

en materia de salud también hay frentes abiertos que nos parece importante poner en valor

cuestiones que solo voy a reseñar programa de protección integral de la salud y prevención en el sistema sanitaria atención a la salud mental especialmente grave en

en materia de igualdad bastantes cuestiones jugosas que no me da tiempo a abordar por un lado sí que queremos señalar la falta de información

que puedan derivarse de la identidad de género de las personas y nos preocupa porque aquí se ha aprobado una ley que requiere acciones en ese sentido por otro lado

con la perspectiva de género que no se está implementando en servicios sociales en relación a la formación del personal la prevención detección de casos de violencias machistas orientación adecuada hacia derechos o servicios y por último

y que entendemos que requieren por parte de las instituciones una apuesta valiente y no voy a terminar sin hablar del departamento de empleo y políticas sociales claro que no a pesar de las mejoras que en las que ya se ha detenido el señor ararteko este departamento tiene el dudoso honor de tener en sus

no aceptadas el viernes pasado escuchábamos al señor belandia diciendo

si se lee la ley reguladora de la institución se dice claramente que el ararteko tienen la posibilidad de dirigir recomendaciones o recordar deberes legales a los órganos competentes a los funcionarios o a sus superiores

o lograr una mejora de los servicios de la administración el propio ararteko señala lo que voy a leer textual las recomendaciones se reservan para supuestos en los que se detecta una conculcación

en el sentido estricto o una omisión muy grave y se requiere que la administración concernida proceda a la revisión de tal actuación recordatorios de legalidad yo vuelvo a escuchar las palabras del señor belandia y o hablamos idiomas distintos o lo que hay aquí

por parte de un departamento que se cree por encima del bien y del mal incluso por encima de las instituciones de control de las que nos hemos dotado

y hacia las instituciones terminar con este alto porcentaje de recomendaciones no aceptadas o sin respuesta del departamento de empleo o políticas sociales seguiremos esperando y mientras tanto

fundamentalmente la persistencia del incumplimiento de legalidad o la vulneración de los derechos ciudadanos impidiendo la reposición
en sus legítimos derechos palabras del ararteko en este informe no mías besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea eh bildu taldearen ordezkaria